voy a ser breve una vez alcanzado este acuerdo que nosotros vamos a firmar y voy a explicar básicamente por qué lo vamos a firmar porque es verdad

de la transparencia o si quieren no llamarlo de la transparencia

de otra forma no pero de la mejor transmisión de datos a la opinión pública

en el seguimiento que hacemos en las comparecencias que todas las semanas tenemos a petición de los grupos que apoyan al gobierno las tenemos todos los miércoles y trabajamos en esas comparecencias con esos datos que se publican

a la valoración sobre si son más o menos útiles su publicación desde luego a nosotros como grupo parlamentario sí que nos parece que serían

a otro tipo de fuentes sobre la misma cuestión en otros ámbitos como son las del ministerio que hay datos que aquí no se dan y que por lo tanto no entendemos que no se den pero nosotros que esto pues yo creo que en la iniciativa

no se ha abordado demasiado finalmente pero sí que hay la cuestión por la que nosotros desde luego firmamos esta transacción sí que nos parece importante porque veníamos también hablando de esto desde el principio de la legislatura la primera vez que tuvo ocasión la consejera de comparecer y explicar las líneas de trabajo del departamento

de los rastreadores y la utilidad de los rastreos

para el tema del seguimiento del virus para saber conocer exactamente los ámbitos de contagio y sobre todo pues le reclamamos

que en el momento del verano cuando el momento anterior a esta segunda ola

en el que estamos era cuando se tenía que haber hecho y que no había ni siquiera número de rastreadores suficientes

un avance y por lo tanto nosotros lo hemos firmado

recoge que sume al equipo de rastreo un equipo de investigación con los profesionales del perfil adecuado encargado de analizar e identificar los ámbitos y las posibles fuentes de contagio porque a nosotros

lo que también veníamos reclamándole diferentes grupos al gobierno

no porque nosotros nos lo hayamos inventado y además escuchamos a los profesionales insistir mucho en esta cuestión y en la importancia de esta cuestión y por lo tanto pues bueno nosotros firmamos el acuerdo y vamos a votar a favor porque no entendemos

viceconsejero en este caso en las comparecencias nos ha contestado él ha hecho referencia la señora ubera a esto

nos ha contestado que no saben

los contagios porque es muy difícil saberlo en el momento en el que estamos de transmisión colectiva claro pero a la vez

que nos dicen qué espacios son seguros los ámbitos laborales el transporte y a la vez nos dicen que ámbitos parecen menos seguros la hostelería etcétera entonces no entendemos muy bien cómo compagina

que sea muy difícil prácticamente imposible nos dijo el viceconsejero conocer los ámbitos de contagio que nosotros podemos reconocer que sea difícil y sobre todo pues con los equipos que ha habido hasta el momento y a la vez

tan categóricos a la hora de transmitir a la gente también cuáles son los ámbitos más y menos seguros por lo tanto nosotros pensamos

que ese equipo de investigación puede ser muy útil en esta tarea

y que tiene la dimensión también necesaria que no sabemos cuál será

es positivo o no que nosotros pensamos que sí besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

pensamos en la enmienda a presentar a esta propuesta consideramos imprescindible

necesarios para conseguir una absoluta transparencia en relación a los datos que se proporciona por parte de osakidetza y el departamento de salud en relación a esta pandemia y en ese sentido pues consideramos que había margen de mejora como

demostrado el hecho que hemos conocido que ayer sí que tengo que decir que recibimos explicaciones de la consejera

de antígenos porque solo se habían computado desde hasta hace dos semanas las últimas dos semanas solo las pruebas de los contagiados por pruebas pcr y en ese sentido doscientos cincuenta y seis ingresos estaban fuera de este recuento esto

grupos parlamentarios que solicitamos explicaciones sobre este aspecto nos señaló que se debía a un error informático

pero creemos que cuestiones como estas no se deben de volver a producir porque obviamente pues en la información que se está dando sobre una cuestión

los ciudadanos y sobre todo pues también los representantes políticos hacemos un seguimiento pues exhaustivo de estos datos para conocer

de la pandemia en ese sentido pues sí que consideramos que había margen de mejora y también lamentamos que al final en el acuerdo de transacción no se haya alcanzado

vistos los últimos acontecimientos y alguno que otro suceso también en relación

salud había posibilidad de introducir alguna mejora en este sentido en relación a la labor de rastreo consideramos necesario que hay que agilizar la realización de pruebas pcr

mejorar la labor de rastreo para detección temprana de contactos directos y no solo los contactos directos sino que nos parece una cuestión también muy importante el poder llegar a las fuentes de infección de la persona contagiada es decir tenemos que tener información suficiente

dónde esa persona ha podido contagiarse porque así también podemos conocer

focos de infección y establecer medidas de control y de prevención mayores para la no transmisión de este virus y por otra parte nos parecía oportuno también introducir una referencia a lo que son bueno la cuestión concreta de reforzar los equipos e infraestructuras de los laboratorios

había problemas en relación a que podía existir un cuello de botella en relación a también a a pues una vez que llegan las pruebas

las labores que corresponden a un laboratorio en esta cuestión bueno por lo tanto satisfacción

una referencia explícita al tema de la transparencia pero no obstante creemos que las cuestiones que se han transado en relación a las labores de rastreo son positivas supone avanzar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

en primer lugar quisiera destacar una cuestión en la que yo creo que todos podremos coincidir la covid diecinueve ha demostrado la necesidad de avanzar en los distintos ámbitos de coordinación para hacer frente a esta y futuras pandemias que podamos sufrir en el futuro

sigue desarrollándose más allá de polémicas coyunturales que con más o menos repercusión mediática hayan podido darse y si me apuran les diré que

de que ese nivel de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en materia de salud crece exponencialmente en los niveles con menor exposición pública y mediática algo que sin duda

es evidente que la rapidez de la evolución de los hechos a escala nacional e internacional ha requerido la adopción de medidas inmediatas y eficaces

la declaración del estado de alarma permitió la adopción de medidas que han conseguido alcanzar gradualmente el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y reducir al máximo

motivo por el que se ha iniciado la transición hacia una nueva normalidad

económicos y de movilidad con las máximas garantías de seguridad sanitaria y en más de una ocasión ya lo hemos dicho

siempre existen espacios de mejora pero no sería justo pasar por alto que el departamento de salud del gobierno vasco viene publicando diariamente los informes sobre la evolución del coronavirus covid hemeretzi y yo creo que eso en sí mismo supone ya

que creo que explicita la voluntad con la que se ha venido trabajando desde el principio

así como múltiples materiales editados y disponibles para toda la ciudadanía a través de un simple clic

y con ello tampoco podemos olvidar toda la documentación remitida por el departamento a petición de cada uno de los grupos parlamentarios así como las comparecencias semanales que a petición de partido socialista y partido nacionalista vasco realiza la consejera gotxone sagardui ante la comisión de salud para dar cuenta de la situación del coronavirus

por lo tanto yo creo que no cabe ninguna duda respecto a esa voluntad de transparencia informativa que se ha venido dando de forma continuada y a mí eso me parece muy importante despejarlo de entrada lo vuelvo a decir hay margen de mejora pues sí como hay margen de mejora en cualquier ámbito

de que se está en un proceso de mejora continua precisamente para facilitar toda la información relevante a la ciudadanía despejado este punto me centro en lo que yo creo que es la parte más sustancial de esta iniciativa y que además creo que nos acerca a todos tal y como han señalado quienes me han precedido

y dos el acuerdo en torno a la necesidad de continuar desarrollando campañas de sensibilización social la transaccional que hemos alcanzado con el grupo proponente eh bildu y con elkarrekin podemos a quienes agradezco su actitud de búsqueda de un acuerdo

con el objeto de aconsejar con las medidas más adecuadas para su contención

sumar al equipo de rastreo un equipo de investigación con los profesionales de perfil adecuado encargado de analizar e identificar los ámbitos y las posibles fuentes de contagio

y por último mantener el trabajo de sensibilización a la población a través de nuevas campañas

ante el virus y en su caso divulgando situaciones reales y testimonios

respecto a que nuestra prioridad respecto al covid no es otra que la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas que podemos tener diferencias y que las vamos a seguir teniendo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

arratsalde on guztioi dos asuntos previos primero una constatación
es la primera vez en esta legislatura que veo que estamos teniendo un debate sereno sobre el covid hemeretzi

digo por el sueño de sus señorías segundo un recado la

y al retrasarse el asunto pues se ha tenido que ausentar

el agradecimiento señora ubera gaur egun

ezetz se ve que el problema ocasionado por el covid diecinueve

ocupara un hiperespacio inabarcable para un intelecto tal sencillo como el mío porque hoy se toca no uno

de un poliedro de infinitas caras que probablemente solo sea una que aparece un virus

llena la atención primaria y los hospitales y lo que es peor provoca una cantidad relevante de fallecimientos y todos los debates que hemos tenido que tenemos y que tendremos giran alrededor de esta incontrovertible verdad

desconociendo cómo funciona cómo infecta cómo se multiplica y cómo nos enferma o cómo no nos enferma a pesar de ese

en todos los sistemas sanitarios del mundo que sobre todo en sus inicios fueron dando tumbos en sus conclusiones por la sola razón de desconocer todo sobre el virus

digo lo que todo el mundo conoce exclusivamente para contextualizar el problema eta euskal osasun publikoak hasierako kolpeari erantzun ondoren

amplió y corrigió para llegar al formato actual que desde casi el comienzo se publicó diariamente y diariamente se siguen publicando los datos más relevantes que nos permitan conocer la marcha de la pandemia en cuanto a infectados hospitalizados o índices que casi nadie entendemos incluso pueblo a pueblo es decir

eso es transparencia y no es un problema de transparencia es un problema del volumen de datos que unos u otros queramos que se publique se hace

ofrecer algunos datos que se han llegado a pedir o no aportan nada o requieren un esfuerzo que no compensa la información que ofrecen además aparte de la publicación periódica de datos

para informar de la evolución de la pandemia sino también para sensibilizar a la ciudadanía

y eso aunque no lo parezca también son campañas de

acciones a las cuales habría que añadir las campañas clásicas de contratación del departamento

siete campañas y ahora la actual genérica de manos mascarilla distancia que precisamente no sé si por convergencia adaptativa a la realidad o por qué cumple exactamente las ideas que trasladaba la proposición original

y el departamento de salud con los problemas de desconocimiento conocimiento compartidos con todo el mundo además de informar de lo que sabía la ciudadanía y publicarlo diariamente y de hacer campañas de sensibilización sobre el modo comportarse

clásica en epidemiología la búsqueda de focos de infección por el método de rastreo

a pesar de las urgencias para todos se montó casi desde el principio

esa red ha ido ampliándose a lo largo del tiempo y ahora trabajan ya en ellas setecientos personas

localizar los contactos y someter a análisis y a cuarentena y otra

lo fundamental desde el principio y a lo largo de esta pandemia ha sido y es retirar de la calle y aislar a los contagiados

todo lo que se ha podido aunque por cierto saber dónde se ha producido exactamente de verdad no necesariamente aporta todo lo que algunos creen

saber dónde se hace que parece sencillo en realidad resulta enormemente complejo pongamos un caso supuestamente fácil

se llama a todos los clientes de los últimos días de ese bar para ver si han sido contagiados se ha hecho varias veces y probablemente algunos den positivo

y se le apuntará en el bar como lugar de contagio es lo fácil es lo que hacen un apunte contable pero no sabremos exactamente si lo fue en ese bar o porque hizo al día siguiente una merienda con un cuñado no lo sabremos

si solo ha estado en un lugar en los últimos cinco días lo que

que es bastante misántropo pero el resto de la ciudadanía en general tiene mucha vida social y lo normal es que haya estado en cinco bares en dos reuniones una con su familia y otra con la familia de su pareja se ha dado algún caso

en que el positivo había tenido ochenta contactos recientes ochenta hasta dónde se puede profundizar para conocer la fuente exacta del contagio eso sí si en un pueblo en un barrio en un bloque de viviendas hay un número elevado de contagios se hace un

que es lo más importante lo fundamental porque pocas posibilidades más hay no obstante

que puedan permitir con una explotación profunda de los resultados intentar averiguar lugares

y constantes de contagio para poder hacer luego un trabajo de prevención

como ya lo ha hecho dos veces la cuestión resulta compleja si no imposible miren

se les dispararon los contagios y la propia presidenta merkel

el ochenta y cinco por ciento de los casos se desconocen dónde se ha producido el ochenta y cinco pues bien ahora con los datos recopilados con el sistema funcionando y sin el estrés del crecimiento de contagios el gobierno va a contratar a expertos que puedan explotar esos resultados almacenados y poder averiguar

pueden permitir sacar conclusiones que hasta ahora no se han podido tener en conclusión

con mecanismos de propagación desconocidos de tratamiento médico desconocido y con efectos sobre el organismo humano también desconocidos y aunque todavía hay muchas incógnitas algo entre todos hemos logrado saber

y aun desconociendo lo que podía estar pasando o lo que podría pasar a veces necesariamente improvisando efectuó un trabajo de primera con profesionales de primera y prácticamente desde el primer momento mostró los datos

sobre el problema y cómo se debe comportar y creó una red de rastreo para luchar contra una pandemia que se comportaba de manera totalmente desconocida todo esto que es lo que pedía bildu en su pnl

que también sé que ha hecho un esfuerzo y espero que esto sea el principio si no de una larga amistad

sí de un cierto consenso en un tema en que la ciudadanía espera eso consenso y acuerdo muchas gracias

que en los momentos de transmisión comunitaria sería complicado hacer o detectar los ámbitos de los ámbitos de

nosotros estábamos oyendo a expertos y científicos decirnos en verano o mejor dicho decirlo al gobierno

para que tuviesen los equipos adecuados en aquellos momentos que no había transmisión comunitaria y que en el caso de euskadi el gobierno vasco tenía un equipo de rastreo muy limitado con fundamentalmente profesionales

eso señor tellería es lo que nosotros hemos venido también diciendo

durante los últimos durante los últimos meses porque escuchamos a los científicos y a los

tiene razón muchas veces cuando dice que nosotros y nosotras parlamentarias y parlamentarios efectivamente no somos los que más sabemos de esto pero escuchamos y porque

que amplíe los mis contactos o aquellos con los que yo consulto

no hemos hablado con los sindicatos esto es algo que están planteando los profesionales y los científicos pues desde hace

euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza si me lo permite desde el escaño

que afinar cuando hablamos del coronavirus porque es verdad como dice el señor tellería que

decisiones en un principio se adoptaron decisiones sobre un escenario que no conocíamos y ayer compareció ante la comisión de salud el grupo de afectados por el oncovid y nos enseñaban otra parte del covid que mucha gente desconoce que es aquellas personas que se han jurado en teoría del covid

que no desaparecen y esta es una enfermedad que estamos aprendiendo a conocer en estos momentos yo creo que

sanitarias están volcadas en todos los países en lo más inmediato que es evitar los contagios del covid pero evidentemente esto nos va a traer muchísimo trabajo todavía por muchísimo tiempo

yo creo que hay que decirlo abiertamente ha sido en base a acierto error porque en un principio no sabíamos

también yo quiero decir que cuando se habla de actuaciones cambiantes tampoco tenemos que cometer el error

dirección esta enfermedad nos ha enseñado que vamos conociendo diferentes efectos y que ante los diferentes estadios

hay que tomar distintas medidas yo también quiero recordar que en este mismo parlamento y en este mismo pleno hace escaso tiempo

países que hoy están peor que nosotros con medidas muy similares a las que aquí se han adoptado

a la que nos vamos a tener que aprender a enfrentar todavía en esa parte de lo inmediato de evitar los contagios y en esa parte de cuáles son los efectos que finalmente pueda trasladar esta enfermedad a

yo creo que para esto es muy importante la concienciación social

que hemos conseguido porque además de estar en manos de los gobiernos que efectivamente en primera mano tenemos que

las decisiones para llevar a cabo estas campañas la ciudadanía también tiene en sus manos protegerse de esos contagios yo creo que el acuerdo que hoy hemos conseguido

de mínimos sí lanza ese mensaje positivo con el que yo quiero

y es que por muchas diferencias que tengamos y también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

eskerrik asko y vaya por delante de nuevo mi agradecimiento a todos los grupos y especialmente a bildu por el acuerdo al que hemos podido llegar

sugerir a la administración que está gestionando un conflicto como este cosas que debe de hacer cuando tiene de golpe de golpe un problemón de gestión y eso no se soluciona solo

hay que ordenar todo el sistema y diseñar algo sobre

poco a poco poco a poco intercambiando información con otros entonces ahora es cuando se va viendo

se viene haciendo sensibilizar con campañas también y el rastreo también

porque en el primer momento lo que ahí importaba era el rastreo rastrear entrevistar

ha habido un día en que hubo mil quinientos treinta y seis casos positivos

otra cosa es quién se pone a procesar eso cuando tenemos otras prioridades hay que priorizar el problema que tenemos y eso es lo que yo creo que se ha estado haciendo a partir de ahora se hará una investigación llámele como quiera investigación realmente es más un trabajo muy profundo matemático informático para explotar todos esos datos y ver

y ver si llegamos a algo no no se llega insisto no se llega tarde a esto se llega en el momento en que se tienen unos datos que nos van a permitir con una cierta calma esperemos que la tercera ola

sin análisis muy profundo y solo con un cierto sentido común de un excientífico como yo se puede concluir que se producen contagios

y no donde hay elementos de control como en las escuelas y el trabajo básicamente es así

hay menos contagios cuando hay normas controladas y más contagios cuando funcionamos bajo nuestra propia responsabilidad individual y social esa es la realidad y en principio no harían falta más números esa es la realidad y sobre esas realidades se toman decisiones a partir de ahí se lo podemos concretar en números en derivadas en algoritmos

porque en el fondo para qué queremos saber cómo se ha llegado a sugerir en esta larga negociación de este puente la tasa de positividad de las personas a las que se realiza pcr

para qué queremos si el que da positivo no va a ingresar ni se le van a hacer pruebas diagnósticas lo van a mandar a casa a que esté diez días y a que vuelva entrará a formar parte de los positivos generales

no lo sé para qué queremos saber el número de aislados no lo sé

por cuatro o cinco cada uno de los casos y nos saldría más o menos pero qué aporta eso

sea inmenso e incomestible es decir nosotros departamento de salud tiene los datos por cierto también se ha citado que en el ministerio ahí hay un problema informático de verdad la base de datos sobre dónde creen que se ha producido esa la tiene salud

que es incapaz de ser volcado a la red renave

de creo que ha sido en el bar creo que ha sido en su casa sin tener un contraste por eso salen esos datos

muchas más cosas en cualquier caso el acuerdo de grupos parlamentarios sin ser imprescindible es muy importante porque saben que ayuda mucho a generar un clima social propicio para asumir que se trata de un problema de todos

pero se soluciona cuando el problema se aborda de un modo conjunto hoy hemos dado un paso y yo creo que se deben dar más y en ello estoy

amable que facilitará estas cosas y yo estoy dispuesto pero

no quiero el tiempo dirá pero hoy en cualquier caso insisto me congratulo con el acuerdo eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna

creo que de actualidad y sobre todo interesante para el bolsillo de muchos ciudadanos y en este caso de muchos ciudadanos vascos sí que es cierto que este gobierno el gobierno del partido socialista y podemos al final accedió

quirúrgicas pero solo de estas mascarillas y no del resto y por lo tanto nosotros hemos considerado insuficiente esta medida que hay que decir que ha venido absolutamente a rebufo de los acontecimientos y tras la presión ejercida

inicial de no rebajar del veintiuno al cuatro por ciento el precio de las mascarillas entendemos que no ha sido

y que afecta al bolsillo de los ciudadanos de todos nosotros de forma muy directa estamos hablando

el gasto en mascarillas de setenta y cinco a cien euros los meses estamos por lo tanto en un tema en la que se ha demostrado la inacción de este gobierno del partido socialista podemos y queda patente también la mala gestión de este

en la lucha contra la pandemia las mascarillas los guantes los geles hidroalcohólicos se han convertido en una herramienta fundamental diríamos que esencial y también al ser obligatorios como se decretó en su momento se han convertido en artículos de absoluta primera necesidad

bajo la excusa peregrina de que una rebaja y leo

sesenta y ocho millónes de euros de recaudación al año es decir

de recaudación al año luego

del veintiuno al cuatro por ciento alegando que no tenía permiso por parte de las instituciones europeas

claramente desmentida por un informe ya de la unión europea del cinco de mayo de aplicaciones del iva a productos necesarios para combatir la pandemia

expresamente en este informe que no se iba a sancionar a ningún país por esta razón y también hay que añadir que bruselas es más no ha abierto ningún procedimiento de infracción a los países que ya han bajado el iva es que hay otros países que ya nos cogieron la delantera

en abril y francia que lo hizo en mayo por no citar aquí también los numerosos países de nuestro entorno en donde está

como decía antes ante la presión las quejas suscitadas y el revuelo generado

del veintiuno al cuatro por ciento el doce de noviembre y se materializa en un real decreto ley el diecisiete de noviembre el real decreto ley treinta y cuatro barra dos mil veinte de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y el sector energético y en materia tributaria pero solo se ha bajado el iva para las mascarillas quirúrgicas desechables

céntimos al resto de mascarillas las higiénicas a las de varios usos a las de alta protección como son las efe efe pe dos no se ha reducido

son las más recomendadas para ser efectiva la protección ante el virus especialmente dirigida a aquellos ciudadanos enfermos

no se entiende que este gobierno el gobierno del partido socialista y podemos mantenga

y que son las más necesarias para la protección precisamente de aquellos colectivos más vulnerables por lo tanto ante la inacción de este gobierno como decía en esta materia hemos creído conveniente mantener esta iniciativa así que tengo que decir

del resto de mascarillas cuyo precio no se ha rebajado sino que pedimos directamente

línea con otros países de nuestro entorno pero esta iniciativa la presentamos el seis de noviembre obviamente estas decisiones han venido después y como ya estaba sobre la mesa la decidimos

creemos que es hora de atender una necesidad ciudadana con rigor como se merece y no poniendo sistemáticamente encima de la mesa que evidencian una falta de voluntad política clara en este tiempo por no citar ya los numerosos errores

nos tiene acostumbrados el gobierno del partido socialista y podemos en madrid por lo tanto hemos presentado esta iniciativa la presentamos en su momento la mantenemos con el objetivo

productos que actualmente todavía no se ha reducido y brevemente paso a comentar el resto de las enmiendas

y la enmienda a la totalidad presentada por una parte por podemos insta a los ayuntamientos que puede estar muy bien pero creo que no era el objeto de la iniciativa inicialmente presentada por este grupo y por otra parte

la enmienda de totalidad presentada por el grupo de bildu instaba directamente al departamento de salud y nosotros creemos que en estos momentos

instar a quien tiene herramientas directas para rebajar un impuesto que como vemos sigue en sus términos actuales

claramente perjudicial para el bolsillo de los ciudadanos y finalmente bueno la enmienda del partido nacionalista vasco quiero decir que aquí señor tellería pues lamento que los esfuerzos

más bien es continuista y se muestra favorable a la decisión del gobierno de españa bueno ya sabemos que ustedes

y podemos pero entiendo que en cuestiones que también son beneficiosas

una sensibilidad especial como es el asunto que en este caso ha traído la coalición partido popular ciudadanos a este parlamento

baliabideak izateko creo que desde el primer momento que empezó la pandemia y

distintas administraciones empezaron a trabajar en solucionar un problema que venía

por ejemplo con las decisiones que se tomaron por parte del gobierno de españa gobernado en aquel momento por el partido popular de desaprovisionarse también del material de protección ante catástrofes de este tipo catástrofes sanitarias y la desaparición por ejemplo de los planes de seguridad nacional por parte del partido popular también del gobierno de rajoy

enorme por parte de la sociedad en su conjunto por parte de algunas empresas y por parte también de comités de empresa de sindicatos que cambiaron la producción en escasas semanas para poder producir mascarillas y otro tipo de elementos de protección y creo que eso habla mucho de las dificultades que teníamos previamente y también de la rápida adaptación

meses y creo que también el gobierno de españa y también el gobierno vasco en ese sentido con la producción de las mascarillas con la colaboración con empresas como el grupo mondragón pues se incrementó la producción

en el estado español son las que producen esas mascarillas que son las que llevamos ahora mismo puestas pero también además de la producción de mascarillas y como diré

y la venta de las mascarillas y evitar el desabastecimiento además como usted sabe desde las distintas administraciones pero en concreto como usted apela al gobierno de españa gobernado por el partido

podemos también hay un fondo de dieciséis mil millónes de euros que se distribuyen a las comunidades autónomas y una de las partidas destinadas dentro de esos dieciséis mil millónes de euros era una partida sanitaria y entre

era la distribución gratuita de mascarillas a la población en general y en particular a la población vulnerable que creo que es a lo que todos y todas nos deberíamos preocupar

desde las primeras semanas un estudio y una vigilancia exhaustiva de los mercados tanto nacional como internacional de la venta

meses y lo que nos consta además que con la colaboración de las autonomías y muchas de las autonomías gobernadas por el partido popular

en el estado y también en euskadi para producir las mascarillas y otros elementos de protección y de y definitivamente y por fin y cuando se pudo y creo que está suficientemente explicado se fijó el importe

el primer importe máximo de cero coma noventa y seis euros que además fue

que llegaba tarde y llegó cuando se pudo garantizar la distribución de mascarillas

alertaban de que podía producir desabastecimiento yo recuerdo el teleberri de aquel día que fue una auténtica locura de distintas declaraciones diciendo que nos íbamos a quedar sin mascarillas al día

desabastecimiento usted hacía referencia también a las distintas tipologías de mascarillas si no la conoce se la puedo hacer llegar hay guía de mascarillas del ministerio de salud y del ministerio de consumo que explican

y todas y las distintas mascarillas que hay y la mascarilla

la más usual es a la que se le ha bajado el ustedes presentaron el día seis de noviembre una proposición no de ley pero es que

de noviembre junto al mantenimiento de la fijación de precios y por qué no se ha podido hacer antes pues por varias razones

y evidentemente desde una formación progresista siempre vamos a estar a favor de la bajada del iva que es un impuesto que es de los más injustos que tenemos

sube la gasolina en las gasolineras cuando baja la gasolina en los mercados no baja en el mismo sentido la gasolina en las gasolineras pues lo mismo con el iva el gobierno de españa cuando tomó la medida tuvo que hacerlo en un momento en el que estaba garantizada la producción de

un aumento de los beneficios de las empresas que producían mascarillas y eso no es

tolerable en una situación como la que tenemos en estos momentos

ante la pandemia y también porque los costes de producción para esas treinta empresas que tenemos en el estado español produciendo mascarillas no son los mismos y también por eso se mantiene

un precio tope para que sea una producción absolutamente rentable y que no produzca perjuicio a las empresas que han asumido esa producción pero más allá de la bajada del iva como usted sabe el doce de noviembre se estableció

además bajó a un cero coma sesenta y dos por ciento

de precios creo que son pasos que se han dado que son importantes pero que además en las mascarillas quirúrgicas sobre todo porque es verdad que las mascarillas

la multiplicidad de modelos y de puntos de venta pues igual no facilita su control el precio de la inmensa mayoría de las mascarillas en estos momentos está muy lejos por debajo

de ese cero coma sesenta y dos pero además nosotros y nosotras además de estas medidas que como su iniciativa hablaba del gobierno

de cosas que sí que también podemos hacer en euskadi además de evidentemente apoyar y de saludar la bajada del iva también pues le instamos al gobierno de españa a que se estudie la bajada del iva de los geles

porque son artículos de primera necesidad en estos momentos y ya se han establecido topes

pero que pensamos que también el iva se podría bajar al cuatro por ciento por ciento por cierto y el veintiuno por ciento del iva de estos productos lo tienen porque lo decidió el señor mario rajoy en el año dos mil doce o sea no fue

en esta cámara y luego también en nuestra propuesta de transacción que hemos firmado con euskal herria bildu pues

el pedirle al departamento de salud aquí en euskadi que estudie la posibilidad de a través de la e rezeta establecer

euros además de bueno pues de seguir trabajando y aumentando los

de dispensación de geles hidroalcohólicos que hemos visto que han sido

en euskadi pero que pensamos que se puede como siempre mejorar en ese tema

todo el trabajo que se ha hecho por las distintas instituciones creo que

de mascarillas está suficientemente explicado y creo que bueno pues la iniciativa creo que murió

gráfica en el momento que el propio gobierno de españa bajó el

mantendremos nuestra transacción y pues como ya está

presidenta bien pues los socialistas vascos pensábamos que

superado como decía el señor martínez zatón cuando el pasado diecisiete de noviembre el consejo de ministros aprobó el real decreto ley treinta y cuatro de medidas urgentes

energético y también en materia tributaria este real decreto ley que se publicaba en el boletín oficial del estado el dieciocho de noviembre y que entró en vigor un día después establece que se mantiene hasta el treinta de abril del año dos mil veintiuno

a las entregas interiores importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la covid diecinueve cuyos destinatarios sean entidades públicas sin ánimo de lucro y centros hospitalarios que hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinte estuvo regulada en el artículo ocho del real decreto ley quince de veintiuno de abril de medidas urgentes

se rebaja temporalmente del veintiuno al cuatro por ciento

de mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de los antes mencionados habida cuenta del uso generalizado que de estas

como consecuencia de la prolongación de la pandemia medida en cuya adopción se considera que concurre el presupuesto habilitante para el recurso al instrumento jurídico del real decreto ley por cuanto se estima precisa su introducción de manera inmediata

que lo que plantea el real decreto y tiene creo a mi modo de ver mayor importancia económica y política la determinación del gobierno de españa de establecer

se produce el acuerdo de la comisión interministerial de precios de los medicamentos

de cero coma noventa y seis euros previéndose que dicho precio se revisaría con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera como así ha sido

a través de esa comisión interministerial de precios de los medicamentos que es un órgano colegiado del ministerio de sanidad del que forman parte además varios ministerios y las comunidades autónomas acuerda bajar un veinticinco por ciento el importe máximo

más de cero coma setenta y dos euros la comisión fijó este precio después de revisar los precios de mercado actuales de las mascarillas quirúrgicas en españa tanto en grandes superficies como en oficinas de farmacia y venta online con objeto de garantizar

y el objetivo era que las personas pudiesen acceder en condiciones económicas no abusivas a este producto sanitario de protección de la salud posteriormente el gobierno acuerda bajar el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas

a sesenta y dos céntimos tras la reducción de ese iva del veintiuno al cuatro por ciento para este tipo de productos se recogiese

de esas medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial al sector energético y medidas tributarias

de acuerdo con lo previsto también en el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios esto no se trata

del ministro o la ministra de turno sin duda alguna

ha facilitado que los colectivos vulnerables pudiesen acceder a estos productos sin que su situación de renta les perjudicase además

del próximo año con la idea de que este horizonte temporal

y la valoración política que hacemos los socialistas vascos es la siguiente el impacto en la economía de la ciudadanía se ha producido con la limitación del precio máximo de venta de las mascarillas

por el gobierno de españa que ha supuesto una reducción del veinticinco por ciento del precio de la mascarilla quirúrgica y si a esta reducción del precio

estamos hablando de una reducción del precio de treinta y cinco coma cuatro por ciento es decir económicamente

se traduce en una reducción del precio en el diez por ciento ha sido más efectivo por tanto reducir el precio máximo que la reducción

esta decisión de reducción del tipo del iva aplicable del veintiuno al cuatro por ciento

por el gobierno hasta que tiene por parte de la comisión europea la confirmación de que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la normativa europea

un incumplimiento de lo establecido por el reglamento de la comisión europea y por rigor y por seguridad jurídica hasta que no se tiene confirmación sobre cómo va a actuar la comisión con españa no se toma la decisión además ponemos en valor la decisión del gobierno de españa

valorados entre trescientos cincuenta y ochocientos cincuenta millónes de euros en función de la duración de la pandemia

y sin ninguna otra medida supondría una mejora del precio para la ciudadanía española en comparación con otros países

está en el cinco por ciento y el precio de la mascarillas es de cero coma noventa y nueve euros noventa y nueve céntimos portugal con un iva del seis por ciento limitó el beneficio de la venta un quince por ciento

lo que suponía cincuenta céntimos la mascarilla y subirá al cinco coma cinco por ciento

y españa con el iva del veintiuno por ciento llegó a setenta y dos céntimos el precio oficial

en esa misma fecha estaba a cincuenta y seis euros la unidad de la mascarilla quirúrgica de ahí que una vez que más queda en evidencia que la medida más importante y de relevancia para la economía doméstica haya sido la regulación del precio máximo de venta de este producto

y por estas consideraciones políticas los socialistas vascos hemos presentado conjuntamente con el grupo nacionalistas vascos una enmienda de totalidad a la propuesta del grupo popular vasco y ciudadanos que viene a indicar que el parlamento vasco ante la crisis sanitaria que estamos padeciendo

a aquellas acciones y medidas en favor de la ciudadanía en la lucha contra la covid diecinueve en cumplimiento de las normativas y directivas vigentes

seguridad jurídica en sus planteamientos porque es su responsabilidad actuar con seguridad jurídica y el parlamento vasco se muestra favorable a la decisión del gobierno de españa

a los productos farmacéuticos que sean de uso obligatorio como son a día de hoy las mascarillas quirúrgicas desechables al menos mientras nos encontremos en esta situación

a la enmienda que hemos presentado conjuntamente con el grupo nacionalistas vascos eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on guztioi la iniciativa que debatimos entendemos que pretende conseguir la reducción del precio de adquisición de estos productos como

y desde luego facilitar su adquisición a toda la ciudadanía máxime teniendo presente además que el correcto uso de estos productos requiere una frecuencia importante de reposición

si bien el partido nacionalista vasco está de acuerdo con el espíritu y el sentido de esta iniciativa y así lo hicimos en el congreso de los diputados apoyando una iniciativa del grupo popular en madrid

vasco y socialistas vascos hemos presentado una enmienda a la totalidad por diversos motivos que a continuación paso a detallar y son cinco la primera

esto para empezar porque no deja de sorprendernos que el grupo popular ciudadanos mantenga este debate cuando el gobierno español ya ha procedido a la reducción del iva de las mascarillas sinceramente pensé que retirarían la iniciativa

el segundo motivo de mi sorpresa es que el grupo popular ciudadanos propone reducir el iva solo a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos pero no a otros productos como los guantes

por qué unos sí y otros no por qué los geles sí y las pantallas protectoras o los guantes no tercero la temporalidad

al menos mientras dure la pandemia y en consecuencia mientras las mascarillas sean de uso obligatorio en cambio la iniciativa del grupo popular ciudadanos no lo contempla en cuarto cuarto motivo son las competencias ni el parlamento vasco ni el gobierno vasco por desgracia son competentes en esta materia y por lo tanto

ustedes son conscientes de ello en tanto que proponen que el parlamento vasco inste al gobierno de españa a ejecutar estas medidas respeten por favor los ámbitos competenciales de cada institución

donde todos los partidos de esta cámara tenemos representación por lo tanto

cuando las iniciativas impulsadas saben perfectamente que no recaen en su ámbito competencial y en todo caso presenten las iniciativas en el momento oportuno que no es este puesto que la medida ya se ha ejecutado en madrid y como quinta cuestión y para cerrar mi argumentario

los centros sanitarios y hospitalarios y que además el gobierno central ya está actuando fijando los precios de estos productos necesarios en la pandemia

son por los que no entendemos las o son nuestros argumentos para presentar la enmienda a la totalidad y eso sí señora garrido sensibilidad tenemos nosotros somos muy sensibles

pues vemos que hay alguna carencia nosotros siempre hemos defendido la reducción del iva a las mascarillas no hay más que ver las intervenciones

en el congreso de los diputados el partido nacionalista vasco siempre ha solicitado esta reducción hasta que se ha conseguido que el gobierno de españa lo ejecute un ejemplo más

nuestras peticiones tienen sus respuestas a esto nos referimos cuando décimos que el partido nacionalista vasco va a españa

otro ejemplo más esan eta egin eso sí nuestras solicitudes van dirigidas a los órganos e instituciones que cuentan con la competencia en la materia que

si el iva fuera competencia de euskadi vería lógica su iniciativa señora garrido por tanto

la modificación del concierto económico para concertar todos los impuestos incluidos los nuevos y que particularmente

luche por un mayor autogobierno en euskadi entiendo que no debería haber ningún problema en que sus compañeros en madrid tanto del grupo popular como de ciudadanos

y creo que no se valoran en esta enmienda de eh bildu mascarillas de un solo uso o reutilizables a todo el mundo o

con pocos recursos por qué no a ciertos grupos de riesgo

o a pacientes hipertensos o con enfermedades cardiovasculares o a pacientes tomando fármacos

por qué no a rentas bajas o rgi las compramos en farmacias de cada pueblo o hacemos una compra centralizada bueno galdera asko

en la primera ola de la pandemia fue ante la dificultad de conseguirlas independientemente de su precio

cuando se consiguen quirúrgicas se reparte a los jóvenes que deben ir a clase eso y bachillerato y a la población receptora de rgi enviándola a sus hogares

para ayudar en su adquisición a los colectivos que están en dificultades económicas y este creemos que es el camino la colaboración y la gestión desde la cercanía hori da gure eredua

ekarrekin podemos taldeko ekimenari dagokionez solicitáis instalar dispensadores gratuitos de mascarillas y geles en los municipios en vuestra enmienda original a este respecto

ayuntamientos y eudel porque que yo sepa esta no es una solicitud que los ayuntamientos hayan efectuado ni es una petición efectuada a eudel por lo que no está encima de la mesa de eudel por tanto el partido nacionalista vasco obviamente apoyará las ayudas de respaldo a los ayuntamientos

en este punto es curioso que siempre se nos pida a nosotros colaboración intercambio de opiniones participación de todos los colectivos pero en esta ocasión nadie ha contado con eudel ni con la opinión de los ayuntamientos

las necesidades locales por tanto a cada uno por favor las competencias que le correspondan eso sí como decía sin perjuicio de que estemos de acuerdo en la iniciativa original del grupo popular

y de apoyar a los ayuntamientos necesidades en línea con lo que en parte solicita elkarrekin podemos amaitzeko eta ez dut amaitu nahi esan barik y que vaya por delante mi agradecimiento a la señora ubera

aunque tal y como ya le trasladé en nuestra opinión su propuesta excedía del objetivo a la iniciativa en línea

le recordaré a los parlamentarios del partido nacionalista vasco cuando salgan a defender sus posiciones e iniciativas i en esta cámara que a cada uno las competencias que le correspondan

pero nos hemos pasado legislaturas y legislaturas instando al gobierno de españa múltiples cuestiones

con eh bildu para instar a cambios en la política penitenciaria acercamiento de presos por no decir el plan ibarretxe que encima no teníamos ni competencia en la propia comunidad

dictaminado en su momento yo esperaba que ya que ustedes van a madrid a defender derechos económicos y sociales pues se les hubiera ocurrido proponer como decía

o las pantallas protectoras pero ya vi que en ese momento de la tramitación de los presupuestos

ocurrió ocuparse de estas cuestiones tan importantes que le parecen en este momento usted bien sabe y los distintos portavoces que han salido

y que las mascarillas más importantes para la protección

más vulnerables se quedan fuera las mascarillas

son las que precisamente usan los colectivos más vulnerables

los organismos los expertos y los organismos que tienen que opinar sobre estas cuestiones son los que nos dicen que son las más adecuadas sobre todo para la protección

frente a los aerosoles yo les invito a que lean los múltiples informes que hay sobre esta cuestión por lo tanto

actualidad y la próxima ya les anuncio que no será la rebaja al cuatro por ciento sino que en línea con lo presentado en el congreso de los diputados será la exención

europea el portavoz de podemos no me hable de la gestión de su gobierno y del vicepresidente iglesias

residencias que precisamente es de su competencia y miren señorías en este tema ha habido

que europa nos iba a sancionar pero cómo que europa nos iba a sancionar

que no se iba a sancionar a ningún estado por esta cuestión y díganme si no países de nuestro entorno

de sanción no sé la carta que recibió la señora ministra pero quiero decir que este informe como digo está fechado con fecha

de cinco de mayo a eh bildu

podríamos recordar no solo las declaraciones de la señora murga podríamos

cuando nos decía que no tiene sentido que los ciudadanos sanos usemos mascarilla

de las mascarillas nos da para capítulo específico dentro del libro

nosotros consideramos que la vía más directa era la de instar directamente al gobierno de españa en esta cuestión porque esta cuestión sí creemos que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos

ciudadanos vascos creemos que el gobierno del partido socialista y podemos claramente ha ido al rebufo de los acontecimientos que se ha demostrado una

asunto absolutamente esencial

sin argumentos al no ir más allá de donde tenía que haber ido en la rebaja

pide nuestra iniciativa mire es un gobierno que cuando la oms declara la emergencia sanitaria el treinta de enero el gobierno minimiza los riesgos tenemos para olvidar aquellas declaraciones del señor illa el veintiocho de febrero cuando nos decía que no pasaba nada y que estaba todo controlado esas las unimos a las del

merecería un capítulo en el libro de la pandemia no solo negaron la pandemia la epidemia sino que minimizaron su gravedad y magnitud oyeron toda las advertencias incluso la de la oms del catorce de febrero

antes de cualquier manifestación concentración no quiero recordar lo que supuso todas las concentraciones que este gobierno y manifestaciones que este gobierno autorizó todos esos días

el siete de marzo una semana antes nos hubiéramos ahorrado mucho daño

sufrimiento en definitiva falta de previsión falta de previsión en la adquisición de puesta a disposición a los ciudadanos que creemos

y como le digo consideramos oportuno impulsarlo en este parlamento creemos que es una iniciativa de actualidad ya le digo que la próxima que plantearemos también por afectar al

no esperamos que la presente el partido nacionalista vasco igual gracias a su influencia la presenta en madrid plantearemos la exención total del iva en el conjunto de

zeren oso argi esaten du estudiar junto a los ayuntamientos y estudiar junto a otras administraciones no dice el parlamento vasco obligará al ayuntamiento de bilbao a hacer nada no dice

entonces me gustaría que se leyeran yo creo que las enmiendas que las intentamos hacer

basada en la coherencia con otras enmiendas similares que se han presentado en este sentido y luego en lo único que voy a estar de acuerdo con la señora laura garrido es que este parlamento vasco puede emitir opinión y puede instar al gobierno de españa a la comisión europea a naciones unidas y lo hace pues prácticamente todas las semanas o todos los meses

insta al gobierno de españa y está firmada por ustedes yo creo que este parlamento tiene competencia para instar solicitar pedir sugerir alegrarse etcétera hacia la institución que considere y creo que además es sano más allá del debate de las competencias en el que habría que trabajar en la en evidentemente por una parte la ponencia

consensos en esas materias otra cosa es luego cómo utilizamos las competencias

en euskadi por ir contestando a la señora garrido o sea ha desviado creo que excesivamente el de su iniciativa a mí tampoco es que me suela gustar mucho

de la política estatal pero creo que las afirmaciones que ha realizado sobre la gestión del gobierno de españa en la pandemia y todo el escudo social y el escudo económico que se ha puesto en marcha pues creo que desatinan

pega tanto de hecho es como de soslayo esto de la gestión de las residencias de pablo iglesias

si digo esto y genero un poco de atención y creo que

esa afirmación y esa campaña de y de bulos realizada por su partido en torno a la gestión

y en particular de mi compañero el vicepresidente pablo iglesias y lo mismo con la afirmación que usted hacía respecto al suministro de materiales

claro es que para eso hay que tener pues cierta memoria de lo que ha pasado creo que hay

marzo abril o no sé desde cuándo que compró material sanitario la comunidad de madrid entonces

con esto creo que el gobierno de españa y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas

han estado trabajando para garantizar lo máximo posible el material y evidentemente ahora lo que no sería justificable en ningún caso sería la falta

no aprovechemos las cosas de los primeros minutos que todos sufrimos todos incluso criticamos y todos estábamos nerviosos y nerviosas

pero para hablar ahora mismo del mes de diciembre por tanto

con la transaccional es verdad que es un texto el nuestro y el de los partidos que apoyan al gobierno que creo que era perfectamente transaccionable pero bueno

con lo que hacemos aquí y en el gobierno de españa pues también nos abstendremos a la enmienda

señorías del partido nacionalista vasco que inste al gobierno de españa a profundizar en las políticas

que está realizando y a mejorarlas y nos gustaría además que esa reducción del iva también

y bueno pues seguiremos trabajando también desde el gobierno de españa desde el parlamento vasco y desde el congreso de los diputados y diputadas para que

sí gracias presidenta en primer lugar señora garrido no se trata de

de euros de lo que podía suponer esa rebaja del iva lo que usted

apartado es que este debate se produce en el marco presupuestario y que por lo tanto es obligatorio el determinar

y que por lo tanto no entraba en el digamos en el estudio presupuestario que se estaba que se había elaborado para los presupuestos generales del estado señora garrido lo importante sigo diciéndolo lo importante no es se lo he demostrado con datos económicos qué supone la bajada del precio

y sin duda sin duda ninguna lo que supone un treinta y cinco un veinticinco por ciento de bajada de precio es la regulación que hace el estado

por lo tanto no haga trampas no haga trampas yo comprendo que cuando uno

determinados debates en otros foros bueno venga usted aquí con el margen que le dan

en su grupo o en su partido político pero desde luego no es verdad lo que usted está contando que no hay voluntad política

pero si antes de que ustedes plantearan la rebaja del iva ya estaba la rebaja del precio de la mascarilla pero de qué está usted hablando en segundo lugar no no había que es un invento de la ministra de turno esto es un invento y la excusa de la comisión europea pues ninguna excusa ninguna excusa mire había una sentencia del tribunal superior de justicia europea

dos mil trece el tribunal de justicia de la unión europea rechaza la tributación a tipo reducido

y hasta que no se hace hasta que no se hace la consulta a la comisión entiendo que

el mantener la seguridad jurídica de todos aquellos actos que realizan

no habrá digamos penalización por esa infracción que se comete porque se sigue cometiendo una infracción el reglamento ni la directiva no ha variado no ha variado

así que hay que asegurarse de que los actos van con la seguridad jurídica correspondiente si no

y entonces sí será una propuesta demagógica en ese caso otra cuestión el tema de los geles porque se me ha olvidado decírselo antes el tema de los geles es que no están catalogados

pero no están catalogados como productos de lucha contra la covid y es necesaria la unanimidad de todos los estados miembros de la comisión para que se pueda

siempre dentro de unos límites en el caso de que haya productos que no figuren entre los tasados expresamente por la directiva europea

en el seno del consejo a propuesta de la comisión europea incluso ante una situación tan excepcional como la generada por la pandemia

no voluntades políticas también tenemos papelitos y también se lo voy a pasar para que lo lea usted

la organización mundial de la salud el treinta de enero avisa de que había que usar mascarillas

en la última comisión para una ponencia de automoción estuvimos aquí una serie de personas parlamentarios y parlamentarias sin ninguna mascarilla absolutamente nada diez de febrero diez de febrero de este año y que esa misma tarde además se convocaron las elecciones

nadie llevábamos mascarillas todos estuvimos tan tranquilos creo que estaba usted también señor otero no en la ponencia de automoción el primer

de los grupos parlamentarios que no estábamos usando mascarilla es decir que la oms vamos nos la traía al pairo poco menos poco menos ocho de marzo

oiga y la segunda ola la segunda ola que estamos padeciendo

ah sí ah vale vale pues nada quédese usted con el ocho de marzo y sigo instándole cambie

le vendrá muy bien y por lo menos pisará realidad nada más muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea jo cuando la señora garrido ha dicho que iba a utilizar

pero bueno que lo mantengo por cierto señora ubera señora garrido ser nueva

pero es curioso cómo se centra usted en el punto de instar al gobierno de españa que es una minimísima parte de mi intervención y no haya respondido a mi pregunta de a ver si tiene usted algún problema en impulsar el autogobierno defender el concierto económico y concertar los nuevos impuestos es curioso que no se haya centrado en esa parte de la intervención arrieros somos y en el camino nos encontraremos señora garrido señor martínez zatón es que tengo tanto rojo parezco mi compañero jon aiartza señor martínez zatón un respeto

de momento justo justo pero sabemos lo que le he dicho es que esta propuesta de revisión y estudio no es una petición y solitud de los ayuntamientos y que no está ni planteado en eudel

el desconocimiento en el funcionamiento de eudel eta

nosotros como ya he dicho antes pelearemos y así va en nuestra enmienda en la que el gobierno de españa para que ante la crisis sanitaria que estamos padeciendo adopte en el ámbito de sus competencias cada uno

en favor de la ciudadanía en lucha contra la covid diecinueve pero siempre en cumplimiento de las normativas y directivas vigentes y contando con la debida seguridad jurídica en sus planteamientos pero nosotros en euskadi debemos hacer nuestro camino y forjar nuestro futuro establecer nuestras políticas públicas nuestros programas de ayudas para hacer frente a la actual

reforzar nuestro autogobierno y tener nuestro espacio en europa nosotros a lo nuestro peleando siempre por una euskadi mirando a europa eskerrik asko eta beste barik eskerrik asko berrojalbiz andrea

diecinueve sobre la infancia y adolescencia que vive en euskadi especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables planes previstos por las administraciones competentes para ello debemos tener en cuenta ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos e hijas menores de edad a cargo priorizando las familias más vulnerables monoparentales entre otras programas educativos dirigidos a niñas y niños con riesgo de abandono escolar discapacidad o en situación de brecha digital

y en las estrategias de movilidad un enfoque de infancia y de sostenibilidad

el cuidado y el respeto del medio ambiente el acceso a los espacios verdes y saludables sin contaminación así como el desarrollo de actividades al aire libre y en la naturaleza espacios protectores donde los niños y niñas puedan aprender a comprender compartir y gestionar

contra todo tipo de violencia viviendas y o alternativas habitacionales al tamaño y condiciones de las familias con espacios comunes para jugar moverse y socializar recursos a las familias para fomentar una parentalidad

la participación de las niñas niños y adolescentes

la adecuación de todos los servicios de detección atención y protección integral contra toda forma de violencia